muchas gracias señora presidenta señoras y señores parlamentarios señor lehendakari miembros del gobierno

bien efectivamente no es un tema nuevo hemos hablado en el parlamento sobre esta cuestión pero sí que es un tema que nos sigue preocupando y la moción que presentamos es consecuencia de la interpelación planteada hace unas semanas

concretamente el pasado día veintiocho de noviembre y que

la normalidad parlamentaria sobre un tema que tiene protagonismo en nuestra sociedad en concreto en el territorio histórico de álava y que preocupa pero bueno en cualquier caso tratando de ser constructivos

de datos y los análisis de las realidades entre el departamento

es palpable es patente hay debate hay discusión hay datos distintos

y en ese sentido no hay más que leer la prensa y escuchar a determinados colectivos de lo que ya hemos hablado abundantemente en este parlamento para ver que tenemos un problema con la seguridad en álava y que parece que necesitamos un plan

pero necesitamos algo más a fondo en relación con estas cuestiones objetivamente cierto y que podemos trabajar entre todos en ese sentido hay una sensación de inseguridad en álava

especialmente en dos mil catorce lo hemos podido comprobar y

es en su responsabilidad es hacerse eco de esa inquietud lo ha querido hacer

de actuar seguir mejorando lo que hay y también no solamente mejorar lo que existe en relación con la seguridad sino

ya lo comentábamos el día veintiocho en la interpelación seguimos preocupados en relación con

las voces que fundamentalmente a lo largo de este año han reclamado una mejor

una mayor seguridad fundamentalmente en el ámbito rural y en las explotaciones en las zonas rurales y polígonos del territorio histórico de álava y eso es un dato objetivo porque todos lo hemos podido ver

escuchar y mucha gente nos lo ha podido desde ámbitos distinto

mejorar y que hay que reforzar sindicatos policiales

de agricultores alcaldes asociaciones de vecinos de álava

se han sumado a una reclamación y a un análisis

reivindicación de necesidades de reforzar la seguridad de mejorar los tiempos de respuesta de aumentar la presencia

caminos en nuestras localidades y pueblos y explotaciones agrícolas ganaderas polígonos de facilitar algunos procedimientos en algún caso

bastantes las cuestiones en las que se ha podido profundizar incidir hemos podido escuchar a personas

y efectivamente el departamento de seguridad ha hecho público recientemente en octubre un plan de reordenación que

las demarcaciones de las tres ertzain etxeas de álava para reforzar la seguridad

álava tiene tres comisarías de la ertzaintza es el territorio más extenso

bizkaia tiene once gipuzkoa tiene once

once comisarías en gipuzkoa tres comisarías en álava de este tema hemos hablado efectivamente

por parte del gobierno pero algo desde nuestro punto de vista

algo está limitado en el territorio histórico de álava en esa cuestión se han analizado se han dado propuestas concretas por parte no de los grupos parlamentarios sino de otros colectivos

especiales situaciones afectadas por un déficit control policial o de la organización interna pero bueno ahí están las cuestiones que parece ser

esa es la clave del planteamiento que nosotros hacemos se han incrementado algunas situaciones en explotaciones agrícolas rurales como diré dentro de un momento y en el momento actual además de las denuncias planteadas por agricultores y habitantes de las zonas rurales y por determinados sindicatos de la ertzaintza se suman las denuncias de agricultores de álava que manifiestan su preocupación por ese aumento de robos en los

explotaciones se han contabilizado por parte de la asociación representativa de los

un aumento de la presencia policial como anteriormente lo hicieron también otros representantes institucionales y los propios miembros

por parte de diferentes personas y ha habido también una posición

del gobierno vasco en esta cuestión de momento hemos visto que esta reordenación nosotros

de conocer los objetivos el pasado día pero yo creo que es necesario que va a ser necesario

en las claves de esa reordenación a través de objetivos a través de medidas concretas

seguir mejorando y arreglando los problemas detectados y existentes

en relación con estas cuestiones y en relación con datos oficiales

robos en explotaciones agrícolas y ganaderas hemos visto que en el primer trimestre del dos mil trece fueron dieciséis en el primer trimestre

dos mil catorce se incrementaron en diez más es decir es un número para ser el primer trimestre muy importante pasando a veintiséis y el dato oficial también de octubre de este año en relación con esas sustracciones esos robos en explotaciones agrícolas ganaderas de dos mil doce

de hirurogeita zazpi es decir un gran aumento también en esas cuestiones

que hay y desde luego que hacen que tanto determinados colectivos asociaciones y sindicatos

se incrementa esa inseguridad no solamente la sensación sino también la plasmación de esas sensación hemos

parlamentario socialista la verdad es que la enmienda de transacción es básicamente la

yo creo que es una iniciativa clara que recoge auténticamente la que

mejora y en ese sentido hay cuatro puntos en relación con la reordenación de la seguridad en álava

complete y adapte el documento de reestructuración geográfica y competencial de las ertzain etxeas de álava

que falta en ese documento para que sea un verdadero plan de seguridad más concreto con objetivos

eso se puede hacer yo creo que no es una losa para el gobierno yo creo que

es el funcionamiento normal yo creo que es perfectamente asumible ese complemento un segundo punto habla de que el parlamento vasco insta al departamento de seguridad del gobierno vasco a dotar

de los efectivos que se reflejan en la rpt correspondiente todos vemos un gran debate

bueno pues que se despejen todas las dudas sobre el número de efectivos de álava

porque efectivamente hay un debate que nosotros queremos que se

la claridad y a través de que se dote de los efectivos

en relación con determinadas denuncias y percepciones y desde luego de lo que son los trabajadores de la seguridad hacemos un tercer punto que habla que el parlamento vasco insta al departamento de seguridad del gobierno vasco a renovar e incrementar el parque móvil adscrito a la comisaría de vitoria gasteiz bueno pues eso es una cuestión que

reconocemos que es cierto y que es necesario y en relación con el cuarto punto

volvemos a una cuestión que no es nueva

que es la reapertura de la comisaría de la ertzain etxea de salvatierra agurain

puede perfectamente organizar los servicios policiales en relación con lo que asumen otras comisarías como es la de vitoria gasteiz o es la de laguardia en relación con zonas de montaña alavesa

alavesa al estar en salvatierra pero zonas que ahora tienen que asumir otras comisarías y pues precisamente esos factores de desplazamiento de posibilidad de y de cercanía harían algo esencial efectivamente sería tener una cuarta comisaría aún muy lejos de las once de bizkaia once de gipuzkoa pero una comisaría que desde luego haría que

cercanía al ciudadano se viese incrementada en algún caso hemos hecho un planteamiento

de estudio de más comisarías pero en cualquier caso hoy por hoy nosotros consideramos que es necesario esta reapertura

esta moción y desde luego esta enmienda de transacción con un ánimo constructivo el de

en relación con estas cuestiones el de despejar las incertidumbres y las dudas que tienen colectivos que nos las plantean y el seguir trabajando yo creo que son cuestiones asumibles yo

yo creo que se podía haber tejido un documento

a la aprobación de este pleno muchas gracias eskerrik asko

en marzo de este año concretamente debatimos sobre la seguridad en las zonas rurales de álava algunos considerábamos y seguimos considerando que no se atendía correctamente y otros pensaban que

en ese territorio histórico era el correcto y que no había que tocarlo

de aquel momento porque hoy estamos hablando sobre un documento concreto en cualquier caso en estos meses el departamento de seguridad ha elaborado un documento titulado

en araba digo yo que

de forma tan inmediata analizando el documento lo cierto es que apunta una necesidad de adaptación pero sin entrar en objetivos concretos

sino que se establece nuevas demarcaciones exclusivamente para las comisarias sin entrar para nada en el segundo rotulo del documento que es el competencial del documento referido se pueden extraer el primero la comisaria de llodio mantiene su actividad sobre un territorio reducido

esta comisaria va a contar con el mismo número de efectivos que son muy próximos a lo que dicta la rpt

entendemos una importante mejora en la capacidad de respuesta pues ya no se va a tener que atender el valle de valdegovía que tiene aun con poca población una gran extensión la comisaria de laguardia incrementa su demarcación territorial con tres nuevos municipios arraia maeztu valle de arana y campezo pensamos

al incrementarse los tiempos de respuesta y los tiempos de desplazamiento por cambio de turnos etcétera pueda haber zonas de la demarcación que pueden quedar durante muchas horas al día desprotegidas

y que ya conocemos que se han arbitrado unas incorporaciones en calidad de comisiones de servicios que apuntan en esa dirección desde nuestro punto de vista los mayores cambios en esta restructuración se relacionan con la comisaria de vitoria no hay cambios sustanciales en cuanto a superficie y población

la incorporación a esta demarcación del valle del valdegovía de esta manera las posibles necesidades de atención a posibles necesidades de actuación y los desplazamientos

se incrementan y pueden dejar como decía antes desprotegidas durante muchas horas

alavesa desde nuestro punto de vista

de este documento es en esta ertzain etxea y sobre todo lo que nosotros resaltamos es lo que se refiere a la rpt una rpt

efectivos pero que se marca como objetivo bajar a quinientos seis es decir ochenta y ocho menos de lo que dicta la rpt que la propia consejera nos presentó

el año pasado el treinta de noviembre de dos mil trece concretamente y

vamos a contar con doce efectivos menos que los actuales entonces por eso digo que

desde nuestro punto de vista se reducen de una manera significativa los efectivos y por lo tanto la capacidad de respuesta de esta comisaría a las incidencias

nosotros sacamos algunas conclusiones a la vista de estos datos para nosotros sigue sin tenerse en cuenta

en cuanto a dotarle de un servicio de seguridad adecuado no se tiene en cuenta la extensión

para los cambios de turno etcétera tampoco se cumple o no se va en la línea de cumplir con un objetivo expresado varias veces por la propia consejera en el sentido de que hay que acercar la ertzaintza al ciudadano porque en vitoria concretamente en esta comisaría si se reducen los efectivos pues no consideramos que

se vaya en la línea de cumplir con ese objetivo no se tiene en cuenta

la propia consejera en este parlamento quizás se considere que debe modificarse y está en su derecho pero o no lo quiere hacer

o no se atreve a sentarse en la mesa de negociación con los sindicatos no sé cuál será el problema pero el caso es que la misma consejera el día

que yo ya digo puede ser modificable por supuesto pero si no se cree en ella si quinientos noventa y cuatro efectivos para la comisaría de vitoria no sirven analícese negóciese y cámbiese el rpt no se mantenga ahí pero en cualquier caso lo que no estamos de acuerdo

que se propone en esto y en definitiva

acaba de aceptar como decía antes que la extensión del territorio a atender no es una cuestión de poner un ertzaina por cada kilómetro cuadrado o uno o unas o más

sino de tener en cuenta la circunstancia de la extensión y de la capacidad

por eso sin más proponemos como ya ha dicho el señor barrio en una enmienda transaccional

que la respuesta a la seguridad en álava se base en la asunción de sus condiciones concretas un territorio extenso y poco poblado pensamos que se debe respetar la relación de puestos de trabajo que tiene como referencia el propio departamento y que por supuesto no se supriman efectivos en las comisarias que se doten a estas comisarias de los medios adecuados

adecuados para desempeñar su labor y también pedimos

una cuestión que tendrá que analizar el departamento pero en cualquier caso una dirección que podía ser compartida con la de vitoria al modo que se está haciendo en otras

de la comunidad consideramos que esto puede ser una buena solución para atender para reducir esos tiempos de respuesta y para reducir esos tiempos de desplazamientos

y sin más creemos que esto son medidas perfectamente asumibles

y que responderían en cualquier caso a una mejor atención a estas zonas a la zona rural alavesa con esas características que tiene esas características especificas
a las que me refiero nada más muchas gracias eskerrik asko unzalu jauna

sí gracias señora presidenta en primer lugar tengo que decir que upyd no comparte determinados discursos catastrofistas o apocalípticos que algunos grupos plantean en relación a la supuesta falta de seguridad

en álava estos discursos no hoy pero sí en el pasado han sido utilizados por determinados grupos políticos y en concreto los utilizó el señor

a esta moción yo tengo que decirle al señor carmelo barrio que no es bueno exagerar las circunstancias para tratar de lograr un objetivo político y creo que es mejor articular discursos más razonados

y más argumentados no compartimos tampoco determinados discursos que giran en torno a determinados agravios territoriales ni que hacen uso del victimismo y tampoco creemos nosotros que álava como territorio histórico sea un territorio maltratado voluntariamente por este gobierno no no creemos en este discurso me parece que

falso que creo que introduce tintes electoralistas

y que no hace ningún bien a la política ni siquiera hace ningún bien a los objetivos por los que este grupo parlamentario en concreto el partido popular

busca lograr dicho esto en fin sí pensamos que seguro que se puede mejorar

en el territorio histórico de álava y seguro que se puede mejorar la seguridad en polígonos y en zonas rurales porque sí que es cierto que determinadas quejas durante estos meses se han producido y por lo tanto nosotros si pensamos que se puede mejorar la seguridad

de álava y escuchados los argumentos de los grupos proponentes y el contenido de esta transaccional lo que se propone en esa transaccional nos parece razonable y por eso votaremos a favor de ella pero estamos más de acuerdo con los discursos que hoy han planteado los grupos que firman esta transaccional que

o apocalípticos que se han venido planteando en el pasado creo que en fin este gobierno no pretende maltratar al territorio histórico de álava ni cosa parecida y decir esto en fin creo que es gratuito y no es apropiado ni correcto en todo caso si nos ceñimos a lo que hoy se plantea

unzalu nosotros sí que estaríamos dispuestos a votar favorablemente de esta
enmienda de transacción que ambos grupos han firmado gracias eskerrik asko

quisiera trasladarle algunas consideraciones que me produce la misma

la misma iniciativa que este parlamento ya discutió en el pleno del pasado seis de marzo y la misma

el once de septiembre y que luego retiró para evitar hacer el ridículo ante el dislate que suponía las distintas posiciones dentro de su partido

respecto de este tema por tanto en esta moción inicial señor barrio como reza el eclesiastés nada nuevo

segunda consideración la comprobación de su escasa calidad democrática porque reitera en todas estas iniciativas que es la obstinación de la consejera la que ha hecho caso omiso a los requerimientos que usted nos trae a este parlamento y lo he citado textualmente

porque no fue la consejera fue la mayoría de este parlamento la que le dijo no

similar propuesta del pasado seis de marzo parece que usted no acepta bien los pronunciamientos mayoritarios de esta cámara puesto que se empecina en traer

un mismo asunto ya debatido así que señor barrio si hablamos de obstinación aquí la única existente es la suya y la tercera consideración es la contradicción interna como antes comentaba

en este tema porque mientras usted nos habla de cómo se ha reducido el número de agentes en el territorio de la necesidad de reforzar

sus compañeros desde madrid recurrían un proceso selectivo de acceso una ope del departamento de seguridad que prevé precisamente

de ciento veinte nuevos agentes por no hablar también de las afirmaciones de su compañero de partido el señor de andrés diputado general de álava diciendo sic no hacen falta más ertzainas en araba sino menos absentismo vamos que poco menos que les está llamando

aquel sofista griego del que ustedes parecen ser fieles seguidores

pueden hacerse dos afirmaciones exactamente contrarias y eso es lo que ha protagonizado el partido popular en este asunto una contradicción total

pero entrando al meollo de su moción consecuencia de interpelación nos describía usted el pasado día veintiocho una situación poco menos que caótica decía que seguimos preocupados por la seguridad en araba ha empeorado

que no se atienden se han incrementado los robos en zonas rurales se reduce el número de agentes en araba etcétera yo creo señor barrio

y es que usted oye pero no escucha y si escucha solo a un concreto sindicato policial lo hace solo a los alcaldes del pp o lo hace solo a determinados titulares de prensa

que el departamento de seguridad le proporciona mire señor barrio vamos por partes

por la seguridad pues debe de ser usted el único preocupado

dicen que la seguridad preocupa únicamente

y ciudadanas incluido por supuesto alaveses y alavesas que además consideran nuestro territorio como sustancialmente seguro

la tarea del departamento de seguridad en un sesenta y siete por ciento segundo tema que usted dice reclamación de sindicatos policiales o alcaldes etcétera se lo decía el día de la interpelación

el departamento de seguridad y las jefaturas de las distintas comisarias mantienen contacto con los alcaldes de manera permanente para analizar los problemas de seguridad que se vayan detectando y tomar las medidas adecuadas

como en operativos específicos por otro lado la propia consejera se ha reunido con la unión de ganaderos y agricultores de álava para evaluar precisamente la situación de seguridad de las explotaciones agrarias y con respecto a las reclamaciones de los sindicatos policiales evidentemente que existen protestas en relación con las condiciones laborales principalmente salariales

la reconvierten en presiones sobre la gestión global del departamento y esa perdone que se lo diga no es ni su tarea ni su responsabilidad la de los sindicatos incremento de robos señor barrio los datos

en el periodo de enero a diciembre de este año dos mil catorce han disminuido en un seis coma cincuenta y cuatro por ciento

representan solo el treinta y cinco coma veinticuatro en lo que vamos de año casi un

el número de agentes en álava se ha incrementado en los dos últimos años más de mil en el territorio uno por cada trescientos veinticinco habitantes

alto de toda la comunidad autónoma vasca de ertzaina por habitante

que se complete y adapte el documento pero si ya

señor barrio lo que pasa es que es un documento de trabajo que está vivo que está vigente y que además

por quien conoce de verdad la seguridad en el territorio y lo de adaptar lo entiendo todavía menos salvo que lo que se está refiriendo usted es a que se siga el patrón

y eso ya le adelanto yo que no no nos gustan las casas cuarteles que se incluyan objetivos concretos de la actuación policial

precisamente señor barrio objetivos concretos que tiene un plan estratégico y que valoran los resultados es decir la mejora continua se aplica en la gestión de la ertzaina que se refuerce la presencia policial

nos dice usted mire la presencia de la ertzaina en las calles y en los pueblos de álava se ha incrementado tanto desde el punto de vista preventivo como desde la investigación se ha mejorado la presencia en la zona rural

en aquellas áreas en que se ha considerado que era necesario hacerlo como precisamente robos en zonas agrícolas o robos en viviendas

importantes detenciones relacionadas con la delincuencia habitual

nuevas sedes policiales ahora lo concretan ustedes cuando firma

mire el modelo de distribución en relación a la población

poblacional es el adecuado precisamente las recientes modificaciones de las demarcaciones

ante incidentes esta es la auténtica realidad señor barrio y no la que usted nos quiere describir lo que ocurre es que al partido popular

no le interesa la seguridad le interesa la crispación le interesa generar un ambiente de falsa inseguridad que justifique luego otro tipo de actuaciones en cuanto al partido socialista en la réplica espero tener más tiempo quiero decirle que obras son amores y no buenas razones señor unzalu una vez más le tengo que decir mire si en el año dos mil doce cuando ustedes

del proponente y el número de delitos en araba era superior al actual y sin embargo el número de agentes en el territorio

todas esas medidas que ahora demanda a los demás explíquemelo por favor por qué no lo hicieron

cada vez se trata más de tener que gestionar contradicciones

señora presidenta señor maneiro

el turno para hacer alguna crítica para meter alguna puñita en relación con bueno pero usted un neocentralista o sea que es normal que eso de

y los territorios no le guste y nos los critique cada vez que pueda pero bueno es igual en cualquier caso es su planteamiento

agradecemos el apoyo ha visto que no he hecho alarmismo en la exposición y la defensa de

en el planteamiento de criterio en comparación con bizkaia y gipuzkoa

rurales como todos conocemos y es normal

con más núcleos aislados y más explotaciones agrícolas y yo le daba un dato objetivo en el primer trimestre de dos mil trece hubo una serie de robos de sustracciones y explotaciones agrícolas y ganaderas en el primer trimestre de dos mil catorce ha habido diez más esto es un dato oficial objetivo es decir en dos mil doce hubo cuarenta y dos en dos mil trece en el total hubo sesenta y siete es decir se están incrementando y si se está incrementando en el primer trimestre de dos mil catorce es que se siguen incrementando los robos en explotaciones agrícolas y ganaderas y polígonos esto es verdad esto es un hecho objetivo o sea esto yo no me lo he inventado estos son datos oficiales

yo creo que hay que hacer caso a eso

vuelvo a decir yo soy correa de transmisión de inquietudes vecinales de inquietudes institucionales de inquietudes efectivamente el planteamiento profesionales o agrarios o de personas que les den en las zonas rurales y que nos lo plantean yo señor agirre como usted soy

y yo desde luego tengo que hacer reflejo de lo que eso es así

en este parlamento usted ha dicho la descalificación suele ser una fórmula retórica habitual suya en relación con los planteamientos cuando interviene

no al revés por traer planteamientos y por no reconocer que es una moción similar hace unos meses fue

como lo valoré como lo vi y tal he traído otra vez con más argumentos y con más apoyos en relación con esas denuncias ciudadanas la cuestión otra vez aquí

que realiza y que aporta el gobierno vasco pero en cualquier caso

como yo decía yo soy representante de los ciudadanos y

leen y nos trasladan cuestiones y mire el gobierno vasco reorganiza la ertzantza en álava con ochenta y siete agentes menos

para la estadística oficial dicho por profesionales no damos abasto

a la señora consejera un relevo de efectivos de lo más traumático los agricultores exigen más vigilancia para frenar los robos se disparan los robos

subida de la delincuencia en vitoria y comarcas como zuia

los vitorianos y los alaveses y estos son cuestiones que salen y que se fundamentan en datos que ustedes les dan por lo que vemos en las informaciones es decir erne reclama dos comisarías más para álava mire nosotros hoy pedimos una más alcaldes de álava piden

en los robos vuelve a hablar de la comisaría de salvatierra es decir la federación de vecinos se suma a las peticiones de más seguridad y que abra dos comisarías más en álava que no lo décimos nosotros son asociaciones de vecinos alavesas

señora consejera de la interpelación que tuve el honor de hacerle

preocupación por la oleada de robos a empresas en jundiz

que sale en relación con lo que son datos objetivos

y dice relatan fuentes de la plantilla de la ertzaintza el panorama actual es alarmante porque a parte de una organización interna muy deficiente

según las patrullas encuestados es imposible llegar a todo además funcionamos por pura estadística para presentar luego en el parlamento y que parezca que todo va genial no lo digo yo no lo dice el partido popular señor agirre lo dicen

en ese punto citan que nos pasamos del orden de dos o tres horas haciendo controles para que luego cuadren las cifras por contra no se patrulla por los polígonos cuando estas bandas actúan y el futuro dicen irá a peor la propuesta de relación de puesto de trabajo rpt de la consejera contempla quitar treinta y ocho plazas

que perciben los ciudadanos y esos son los datos que yo como parlamentario tengo la obligación de traer a esta cámara y que las cosas se arreglen muchas gracias

mire señor agirre es que yo ya es la segunda vez en este pleno

a tres años y pico casi cuatro años de gobierno socialista

más de treinta de gobiernos de pnv

que ustedes generaron durante tres décadas anteriores

en este caso concreto ustedes más de treinta años en la gestión de la ertzaintza tres

el partido socialista gestionando y en esa legislatura del partido socialista fíjese usted lo que se hizo completar con doscientos cincuenta agentes más que estaban ya pactados con el ministerio de interior que ustedes en las anteriores legislaturas no habían cubierto doscientos cincuenta plazas qué se hizo en esa legislatura con el consejero del partido socialista en interior

delitos en álava de una forma significativa que ahora sigan reduciéndose nos congratulamos de ello pero el descenso de delitos en álava se inició en la legislatura pasada y esos son datos objetivos y en cuanto a gestionar la ertzaintza pues mire le voy a decir teniendo en cuenta que en estos momentos es un organismo donde se puede dimitir de la jefatura y seguir mandando pues cualquier cosa pero no es nuestra intención gestionar la ertzaintza ni mucho menos y señor arzuaga nosotros no estamos pidiendo

como mucho estamos pidiendo que se cumpla la rpt que el veinte de noviembre del dos mil trece nos presentó la consejera en este parlamento

unos números que ellos mismos consideran que son los adecuados para cubrir las necesidades de seguridad pública en la provincia de álava eso es lo que estamos diciendo simplemente y lo que no queremos es que si la rpt de la comisaría de vitoria pone quinientos noventa y cuatro si entre los años dos mil once dos mil doce

no se baje a quinientos seis como lo plantea el último documento del departamento de seguridad eso es lo que estamos diciendo

a la hora de organizar la seguridad en álava la especificidad del territorio que aquí ese ratio de

ertzaina habitante no vale no vale por qué porque es un territorio menos poblado más disperso

por las distancias a recorrer son mayores y por eso creemos que tiene que haber más efectivos fíjese usted en marzo discutimos estos y nosotros el grupo popular y nosotros

los efectivos en la comisaría de laguardia sabe por qué no pedimos hoy eso porque ya se ha hecho o sea fíjese votaron en contra ustedes y ustedes de que no se incrementase

los ha incrementado por eso no décimos nosotros no hemos dicho que se incremente nada en laguardia porque ya se ha hecho

aquello y hoy se ha hecho entonces el asunto

usted se ha referido aquí a la comisaría de llodio si nosotros hemos dicho que está perfecta y es más

que efectivamente esa nueva demarcación incluyendo una zona periférica del valle de ayala pues que mejora claro que mejora porque el tiempo de respuesta es menor porque son poblaciones urbanas porque también hay más policía municipal

o sí señor ramírez escudero no hay policía municipal en el ayuntamiento de valdegovía

que en las zonas rurales de álava es más difícil complementar con las policías municipales porque no existen porque no existen en vitoria sí pero no existen en el valle de arana tampoco

no hay policía municipal son zonas donde hay que atenderlas de una manera diferente eso es lo que estamos diciendo nosotros insisto

si se tiene que negociar la rpt que se negocie con los que tiene que ser pero que no se nos venga

y ahora se diga no los efectivos van a ser quinientos seis y qué es lo que pasa

cuando insisto dos mil once dos mil doce hubo hasta quinientos treinta efectivos en la comisaría de vitoria

hacer más eficientes los recursos que tenemos que ya sabemos que son escasos pero hacerlos más eficientes eso es lo que estamos pidiendo

después de la discusión del debate de marzo se incrementó la plantilla

eskatzen baina esaten da creemos que debe haber más efectivos se debe incrementar la dotación en algunas comisarías

para perderla no se quiere mejorar la seguridad en araba porque en araba no hay un problema acuciante y grave de seguridad

enarbolando la inseguridad en araba se trajo hace nueve meses por el señor carmelo barrio se presentó una proposición no de ley que hace unos días se retiraba para verse sustituida ahora por esta nueva moción cuatro iniciativas que creo que no se ven

porque se está buscando consenso entorno a una causa justa sino que lo que considero es que se está dando un patrón se ha diseñado una campaña de campaña que no es lo mismo pero da igual de la misma manera que el señor maroto tiene una campaña tiene una cruzada personal contra los inmigrantes en gasteiz a su imagen y semejanza entiendo que también se está poniendo carnada en el anzuelo de la inseguridad rural alavesa puro enganche electoral guerra al inmigrante en gasteiz guerra al delincuente aunque este sea ficticio en el sur

y les entendemos y podemos entender que agricultores ganaderos productores de este medio estén preocupados porque se produzcan robos lo entendemos

que es motivo de agravio el hurto el robo la violencia sobre las cosas no es justificación suficiente para exaltar

sin datos ni cuantitativos ni cualitativos sin números y sin realidades preocupantes que es las que adolecen su iniciativa y como parece que los datos no le ayudan para poder hablar de una seguridad real usted trae presuntos datos

en una seguridad percibida en una seguridad percibida que me imagino que será la que usted percibe o la que perciben los periódicos que usted lee

de inseguridad porque pretende entendemos sacar otro tipo de rendimientos

no se dé cuenta de tan burdo intento y en cierta manera caiga en esa dinámica apoyando esta enmienda transaccional

dice señor unzalu que no hay municipales en algunos municipios del sur de este herrialde pues será porque

una policía municipal y de que se gasten recursos municipales en esa cuestión porque tendrán otras prioridades y parece que eso también sucede

donde sus representantes políticos dicen que no van a invertir en policía municipal entonces en cierta manera trasladan un problema que ellos verifican lo trasladan

tal vez para que lo resuelva otro están en su derecho y según reivindica también en su obligación

con esas necesidades lo único que digo es que gobernar es tomar decisiones y cuando se adoptan decisiones lo que pedimos también es que se cumplan espero usted dice que tal vez con esta iniciativa

otras zonas a la de agurain etcétera yo lo que espero es que con esta iniciativa si de verdad ser verifica que hay una necesidad de seguridad en esos municipios sus representantes municipales

un municipal un policía municipal en un pueblo de

habitantes la otra vez

a vivir con miedo hoy no puedo decir esto no me puedo poner tan épico porque es evidente que se hace con otros propósitos se ve cuál es el interés es señal de identidad del partido popular

más atribuciones para ella más código penal y más severo más ley de seguridad ciudadana más ley de seguridad privada más negocio de seguridad más populismo securitario o punitivo frente a ello

de identidad de eh bildu no poner algo tan serio como son las políticas de seguridad en manos exclusivamente de más policía eskerrik asko

bai señor barrio observo con tristeza que usted sigue oyendo pero que no sigue escuchando los datos que usted nos ha aportado como yo le decía en mi primera intervención

son todo titulares de prensa son todo titulares de prensa por lo menos lo que aquí nos ha mostrado

de determinadas inquietudes de sindicatos policiales agrarios pero es que los demás también o se cree usted que nosotros no hablamos con el sindicato agrario se cree usted que nosotros no hablamos con alcaldes en álava hombre no se usted

ejercicio de correa de transmisión yo no lo he querido descalificar simplemente le he dicho lo hemos reiterado distintos portavoces hasta usted mismo que es la cuarta vez que trae un tema similar

este parlamento y que el parlamento se ha pronunciado claramente al respecto bueno pues usted puede seguir ya se ha dicho en alguna otra ocasión aquí como paco martínez soria

en su perfecto derecho yo no le voy a reiterar señor barrio por enésima vez yo creo la contundencia de los datos

el departamento de seguridad porque están sobre la mesa lo único le haría una pregunta

qué piensa que el departamento que la consejera le está mintiendo me gustaría que me lo dijera si sí o si no

porque para mí eso sería determinante mire usted tiene todo el derecho del mundo se lo decía antes a persistir en su obcecación

que la democracia es la necesidad de aceptar de vez en cuando las razones de los demás

claro por supuesto que nosotros hemos gestionado durante casi treinta años el departamento de interior ahora de seguridad en el gobierno y ustedes tres pero es que nosotros

de plantear este tipo de temas que usted nos plantea nunca los plantea usted y a mí me parece que si tienen esa preocupación en tres años han tenido tiempo

no sé por qué no lo han hecho me dice usted que en el año dos mil doce cuando ustedes gobernaban que el número de delitos descendió por supuesto que sí si yo no se lo voy a negar pero reconózcame usted también que en el dos mil catorce cuando gobernábamos nosotros hay menos delitos que en el dos mil doce

ya tenía asignada más patrullas y se lo dijimos precisamente en el debate que

planteaba que se dotará con seis patrullas más pero me decían al mismo tiempo sí si usted firma la transacción

tienen ustedes a la hora de plantear determinados temas mire en relación a la rpt usted debe saber que el gobierno socialista

unidades centrales no tenían plazas en la rpt más allá de una por categoría y se dotaban de personal

de miñones resultando unas rpt para estas últimas unidades absolutamente sobredotadas para las necesidades reales esto es lo que está arreglando ahora el departamento de seguridad

asignando plazas en relación a la necesidad de cada una y asignando a cada ertzaina una plaza

en propiedad por cierto que esta es una reclamación sindical que también sobre un derecho laboral además

en cuanto al parque móvil parece que solo les interesa gasteiz a mí me interesa gasteiz me interesa araba y me interesa euskadi

en los presupuestos del dos mil quince hay partidas para la renovación de una parte de la flota de los vehículos policiales y sobre la ertzain etxea de agurain y termino podían haberla reabierto ustedes

pero mire le voy a decir una cosa señor unzalu la reapertura o la apertura de un nuevo centro integral una comisaría significaría

de seguridad ciudadana que es el número mínimo necesario

relegarlos para funciones puramente administrativas o de seguridad interna ante esa disyuntiva yo prefiero
más patrullas en la calle señor unzalu eskerrik asko

consecuencia de interpelación que tiene como objetivos los siguientes

existente a día de hoy impedir la corrupción política en el futuro y regenerar la democracia tanto en euskadi como en el conjunto

muchas cosas por hacer muchas medidas que implementar y muchas reformas legales que poner en marcha menos estar de brazos cruzados las lágrimas de cocodrilo ya no son suficientes pedir perdón no basta lo que hay que hacer es poner en marcha

no se han querido habilitar se necesitan por lo tanto hechos no solo palabras y nuestra moción contiene quizás no todas pero sí las medidas principales que en opinión de upyd deberían ponerse en marcha cuando antes para lograr los objetivosseñalados

la trayectoria política de upyd y el desarrollo de su trabajo parlamentario tanto en el congreso de los diputados como en este parlamento percibirá fácilmente que son

las medidas que hemos venido defendiendo durante todos estos años y comprobará también que muchas de ellas quizás la mayoría de estas medidas las hemos venido defendiendo

recibiendo como respuesta política por parte del resto de partidos políticos no solamente

sino el insulto y la descalificación insultos y descalificaciones que hemos recibido especialmente cuando hemos defendido determinadas medidas como las siguientes

del aforamiento que acusados formalmente o imputados por corrupción política no puedan formar parte de las listas electorales de los distintos partidos políticos

que el enriquecimiento ilícito de los cargos públicos sea delito en el código penal la despolitización y la profesionalización de los principales órganos reguladores nacionales

del mercado de valores podemos acordarnos del caso bankia la despolitización y la profesionalización de los tribunales de cuentas y en concreto también en este caso del tribunal vasco de cuentas públicas o la despolitización de la justicia en españa del consejo general del poder judicial órgano parasitado por los partidos políticos tradicionales que como si fuera una tarta se lo reparten les invito

y observen el cúmulo de insultos y descalificaciones que hemos recibido en el congreso de los diputados o en la asamblea de madrid e incluso también en este parlamento

algunas de estas iniciativas insultos y descalificaciones semejantes a los recibidos cuando también en su momento hace algunos años pedimos en diferentes instituciones la limitación de sueldos de concejales y alcaldes que cobraban y cobran sueldos superiores

de su propia comunidad autónoma cosa parecida nos ha venido ocurriendo al defender determinadas iniciativas para la regeneración de la democracia que ahora

por otras formaciones políticas antes nos insultaban y ahora algunos de los partidos políticos tradicionales incluyen algunas de estas medidas

de fin de semana en fin los ejemplos son decenas y están a su disposición en el canal youtube para que puedan asistir a los insultos que upyd

la corrupción política está institucionalizada en españa y es sin duda uno de los problemas más serios que padece nuestra muy mejorable democracia

a nuestra portavoz en el congreso de los diputados cuando subrayamos la corrupción política como uno de los males de la democracia española la negativa del

a reconocer los hechos a decir que no era para tanto la cuestión este debate se produjo hace tres años

venía a decir y a responder que la corrupción política en españa no era para tanto

de nuestra democracia una vergüenza para la ciudadanía y una losa también para salir de la crisis que todavía padecemos hoy ya nadie o casi nadie duda de que la crisis en españa no es solamente económica sino principalmente social institucional y política no porque la política esté en cuestión sino porque lo que está en cuestión es la vieja política y las viejas formas de hacer políticas y las aptitudes de los partidos políticos

hasta aquí y nosotros pensamos que para salir de esta situación son necesarias medidas políticas la mala política se corrige con buena política

se corrige con buena política con medidas concretas para regenerar la democracia y medidas de lucha contra la corrupción política y en favor de la transparencia y basta evidentemente con voluntad política

pujol bárcenas la trama gürtel los ere en andalucía los sobresueldos del pp bankia las tarjetas opacas de caja madrid o el penúltimo episodio de apropiación indebida y latrocinio dirigido por el número dos en madrid francisco granados han situado este problema como el problema que más repugna a los ciudadanos hablamos de casi

y ciento setenta condenados en una sola legislatura si bien la inmensa mayoría de los condenados en prisión la sensación de impunidad es generalizada y el deseo de la ciudadanía creo que es perfectamente diáfano que los corruptos ingresen en la cárcel y que devuelvan el dinero que nos han robado

upyd señaló a la corrupción política y la opacidad de las principales instituciones como uno de los principales problemas a resolver a través de medidas para impulsar la regeneración democrática y luchar contra la corrupción hemos puesto en marcha iniciativas internas

instituciones donde tenemos representación un amplio abanico de medidas para luchar

la mayoría de las cuales ha venido siendo rechazada por la mayoría de los partidos políticos y también hemos puesto en marcha efectivamente cuando no nos ha quedado otro remedio querellas para hacer justicia presentamos aquella interpelación que da lugar a esta moción porque

y preguntado por el asunto el lehendakari se mostró muy preocupado

un pacto de estado contra la corrupción que aborde desde una perspectiva de liderazgo institucional el problema

las bases éticas de una nueva cultura que dignifique la política me pongo a disposición de quien quiera abordar una reflexión sobre un cambio de cultura política

las malas prácticas que afectan a todos los órdenes de la vida a partir de ahí nuestra interpelación y consecuencia de aquella interpelación esta moción

muy dispuesto para hablar de esta cuestión a pesar de que hoy no está no está en el debate de hoy no le interesa al lehendakari escuchar que es lo que se dice en relación

responder sobre un caso muy sospechoso como en el caso pinosolo hoy se ausenta llegue en próximos minutos pero en todo caso nos parece que es un asunto de extraordinaria importancia y como digo nuestra moción esta moción que comienza planteando que este parlamento rechace la lacra de la corrupción política por ser una práctica inaceptable que repugna e indigna a la ciudadanía por lo que el propio parlamento

se compromete a impulsar todas las medidas que sean necesarias para prevenirla proponemos que este parlamento inste al gobierno vasco y se comprometa el mismo

a través de las medidas legales o actuaciones que correspondan uno dotar a la fiscalía del país vasco de los medios humanos técnicos y materiales necesarios para luchar eficazmente contra la corrupción solicitar a la fiscalía general la creación cuanto antes de la figura de un fiscal anticorrupción

impedir que los acusados formalmente por un delito relacionado con la corrupción integren las candidaturas electorales de los partidos políticos en euskadi y en su caso ostenten el grupo socialista en este punto acertadamente habla de cese de todos los cargos públicos a los que se les decrete apertura de juicio oral

quede claro que compartimos la redacción planteada por el grupo socialista también planteamos suprimir la institución del aforamiento porque consideramos que todos los ciudadanos deben de ser igualmente tratados

que todos los ciudadanos deben recibir el mismo trato y que el aforamiento supone una excepción del principio de igualdad una diferenciación y una distinción

para acabar con los aforamientos y a pesar de que el gobierno de españa dijo que no había consenso suficiente no

reducción al menos de los aforamientos existentes en españa también proponemos prohibir y perseguir el nepotismo y el patronazgo en los nombramientos de cargos

y mejorar la regulación del conflicto de intereses de los miembros del gobierno y altos cargos y regular para impedir las llamadas puertas giratorias y establecer

confidenciales y aprobar nuevas medidas de transparencia semejantes a las que ya existen en los países más avanzados de nuestro entorno y reformar también el reglamento del parlamento vasco para que incluya la obligatoriedad de hacer públicas las nóminas y las declaraciones de bienes de los cargos públicos así como otras medidas de transparencia evidentemente esto lo trataremos en los próximos meses en la ponencia correspondiente pero

que es necesario avanzar en esa línea también

y al gobierno de españa a impulsar urgentemente una serie de medidas como aprobar reformas legales para asegurar que los acusados formalmente por un delito relacionado con la corrupción

candidaturas electorales y en su caso seguir ostentando cargos públicos en este caso como decía antes la redacción planteada por el grupo socialista la compartimos y nos parece

más eficientes contra la corrupción que incluyan la regulación del delito de financiación ilegal de los partidos políticos es decir que la financiación ilegal de los partidos políticos

sea también delito a día de hoy no lo es aunque pueda sorprender entre otras y reforzar la exigencia de responsabilidad por mala gestión a los cargos públicos al frente de órganos sociedades o entes públicos que

contrarios a la ley y modificar el régimen de indultos vigente para limitar su aplicación y arbitrariedad en su concesión y la prohibición en determinados como los relativos a la corrupción política e impulsar todas las reformas legales necesarias para suprimir los aforamientos y garantizar

autoridad sancionadora y profesionalización de los organismos reguladores y de control público y avanzar en la reforma de la ley orgánica

los partidos políticos saquen de los órganos jurisdiccionales sus manos y podamos dar pasos para la despolitización de la justicia les enseño lo que hemos venido en llamar el cuadro de la vergüenza

del poder judicial que está repartido entre el partido popular el partido socialista obrero español izquierda unida

será imposible acabar con la corrupción política y modificar la ley orgánica de partidos políticos a fin de obligar a los partidos políticos a avanzar en medidas relacionadas con la transparencia

el pernicioso fenómeno de la puerta giratoria es seguro que caben otras medidas más allá de estas pero en todo caso entendemos que estas son sin duda alguna

hechos no palabras ni lágrimas de cocodrilo ni propósitos demagógicos y falsos de enmienda y es seguro que la situación actual de corrupción institucionalizada hemos llegado a ella como consecuencia de que los principales partidos políticos no solo un dedo para acabar con esta lacra sino que la han practicado y fomentado protegiendo a sus propios corruptos en lugar de denunciarlos apartarlos echarlos y evidentemente también en euskadi existen casos y se han producido casos de corrupción política y existen a día de hoy casos que están siendo investigados por los tribunales de justicia y

aclararse cuanto antes podemos hablar del caso de miguel del caso balenciaga

ibarzarra del caso pinosolo de las noticias pagadas por el gobierno vasco en fin y muchos más que tengo yo documentación suficiente y estoy archivando materia en relación a esta cuestión asuntos turbios que deben aclararse cuanto antes

estoy fuera de tiempo pero quiero decir y mostrar

a tratar de llegar a algún acuerdo transaccional entre los diferentes grupos apenas he tenido tiempo puesto que las enmiendas se presentaron ayer y las he conocido

pero en todo caso en el caso de que hubiera algún partido político que estuviera dispuesto a firmar algún acuerdo transaccional nosotros estaríamos dispuestos

plantea la creación de una ponencia nosotros no lo vemos pensamos que hay que pasar de las palabras a los hechos y que hay medidas concretas que deberían aplicarse ya o pedir a los diferentes gobiernos que las impulsen en relación a eh bildu hay alguna medida que plantea que puede ser interesante

la enmienda del partido nacionalista vasco es prácticamente la nada porque no plantea nada y en relación al grupo socialista le he planteado una posible enmienda de transacción

una enmienda de transacción que recogiera lo que el grupo socialista plantea para el gobierno vasco

el asunto de la independencia judicial el tema de los aforamientos la reforma del código penal y algún otro que usted tiene en todo caso nosotros pensamos que estas son medidas que deben ponerse en marcha cuanto antes para acabar con la corrupción política y regenerar cuanto antes la
muy mejorable democracia que tenemos eskerrik asko maneiro jauna

gracias presidenta buenos días señorías

aunque el señor maneiro siempre ha afirmado que la política es el arte de lo posible

existe un amplio consenso en definirla como esa ciencia que trata del gobierno y la organización de las sociedades humanas pero de cualquier manera

incluso la del ejercicio del poder a nosotros a los socialistas nos parece para empezar una actividad digna del máximo respeto en política como en casi todos los órdenes de la vida yo aprendí lo que sé de otros que a su vez lo aprendieron de otros

para que este país que es el suyo el mío el nuestro el de todos sea infinitamente mejor de lo que fue

esto se ha hecho única y exclusivamente por la política si tenemos

una educación universal si tenemos o teníamos servicios públicos una red de cobertura del desamparo y todas esas cosas por las que hemos estado orgullosos tanto tiempo

no se hace sola señor maneiro la política la hacen mujeres y hombres que han trabajado sin descanso para mejorar nuestra vida para mejorar

los problemas que plantean nuestra convivencia colectiva así

es reivindicar la política y por lo tanto a todos esos ciudadanos y ciudadanas que legítimamente elegidos por otros ciudadanos y ciudadanas nos representan a todos

defienden el interés general y el bien común dicho esto quiero recordar que no es la primera vez señorías que debatimos sobre este asunto el señor maneiro tiene una especial querencia a la reincidencia y eso nunca es bueno

por eso hay que tener cuidado con repetir muchas cosas porque al final eso cala y hay que tener mucho cuidado de todas maneras le voy a decir una cosa está

si la razón por la cual usted actúa como si fuera

fuera a buscar soluciones y no dar el meeting de turno

trae a esta cámara la corrupción o trae algún tema para hablar de la corrupción no es la de plantear propuestas con la buena fe del que pone alternativas o soluciones

para que quede claro clarísimo como el agua clara que todos aquellos partidos que tienen más de siete años de existencia es decir todos aquellos partidos menos el suyo que tienen historia recorrido y por lo tanto responsabilidad y la han ejercido tienen corrupción y usted

y eso no puede ser upyd siempre ha tenido la clave para resolver el problema de la corrupción y por eso trae aquí

y sin nada sustancialmente nuevo de lo que ya hemos debatido en esta cámara y en lo que hemos debatido también en el congreso de los diputados trae asuntos que ya hemos solventado hace bien poco

como usted lo sabe perfectamente de hecho ha hecho una referencia a ellas y sin embargo insiste e insiste para upyd todo lo viejo es malo todo

ahí tiene usted a su presidenta que es una señora que lleva treinta años en política y todavía no la había oído hasta ahora absolutamente nada de eso

y también pidió que esa fiscalía contara con recursos suficientes y este parlamento ha conocido recientemente que esa demanda que salió de este parlamento ha sido atendida por el consejo fiscal y ahora lo que queremos es concreción en esos recursos siguiendo las de la propia fiscalía este parlamento también ha regulado las incompatibilidades por una ley que ha propuesta del grupo socialista se aprobó este año también lo ha dicho

usted votó y respaldó aquella ley hace tan solo seis meses

en breve de regular la transparencia y lo vamos a hacer a través de ese proyecto de ley de la administración pública vasca mejorándolo sustancialmente

está en revisión esto en la correspondiente ponencia a la que también ha hecho referencia en la que usted participa y en la que ha hecho usted sus aportaciones que ese tendrán en cuenta como las del resto de los grupos

públicos ya se dan o las relativas a las contrataciones a las que se accede a través del perfil del contratante en fin todas esas cuestiones que obviamente no solamente se pueden mejorar es que se pueden mejorar mucho y ese debe ser el camino y eso es

penal como del código de enjuiciamiento criminal etcétera pero no importa todo esto señor maneiro usted pide porque todo esto le sirve para justificar esta lección que tiene que darnos a todos hoy

usted que es el proponente de esta iniciativa viene aquí a disertar una vez más para ganar una par de titulares para forzar un titular que diga ustedes se niegan a y eso no puede ser

por ejemplo no le exime de disfrutar por ejemplo en cuanto al aforamiento por ejemplo

supuestos privilegios con los que dice querer tener y que supuestamente tenemos y a los que tras seis años de ocupar ese escaño no tenemos conocimiento señor maneiro que haya renunciado

disfruta trayendo este tipo de debates y reiterándolos

sin cesar si usted disfruta yo encantada de la vida sobre hojuelas solamente le voy a decir una cosa la experiencia y la vida lo que dice es que constituirse como el portavoz absoluto de la actividad política

tanto énfasis normalmente suele venirse en contra porque cuando uno llega a tener en realidad la posibilidad de ejercer algunas cosas

disolver tan fácilmente yo prefiero creer centrarme en lo que los socialistas creemos y nosotros creemos en el ejercicio de la política como una forma de compromiso

dedicación y una retribución acorde creemos que quien ejerce la política o cualquier otra prestación de servicio público debe rendir cuenta de cada euro que recibe fundamentalmente porque

el dinero de todos con los impuestos de todos nosotros también creemos que deben existir todos y cada uno de los controles que sean necesarios y en su caso sanciones pero debe existir sobre todo prevención decencia y claridad y esto solamente en esto coincido con usted lo garantiza la transparencia no

en denunciar la corrupción y exigimos rigor en el castigo pero exigimos también rigor en las acusaciones y en eso es lo que creemos los socialista a pesar de que haya algunas intervenciones reiteradas

a hacer mella en que hagan creer que la ciudadanía que la política es algo sucio no lo es

y le he dicho lo que creemos y ahora le voy a decir en lo que no creemos no creemos en parlamentos que estén formados por tercios

a la función pública pero tampoco creemos en órganos de representación en manos de quienes dicen no necesitar el sueldo que nos pagan los ciudadanos quiero recuperar aquí cosas que oímos cuando se aprobó la ley que regula la conducta del cargo público y el régimen de incompatibilidades porque le vuelvo a recordar que efectivamente lo aprobamos se hizo un repaso de cada uno de los setenta y cinco parlamentarios que nos sentamos aquí

de veinticinco profesiones diferentes nos sentamos sociólogos químicos

de escuela y catedráticos universitarios baserritarras auxiliares de farmacia politólogos médicos inspectores de trabajo emprendedores con empresa propia obreros animadores socioculturales hay de todo como en la viña del señor nos sentamos

otros con estudios primarios nos sentamos funcionarios autónomos trabajadores por cuenta ajena algunos han desarrollado su labor

otros dedicarán esta función solamente a una parte de su vida y luego volverán a su baserri volverán a su despacho

a su comercio y de esto hay en todos los grupos sin excepción y nosotros miramos este parlamento y no vemos nada distinto de lo que ocurre en la sociedad nada señor maneiro aquí hay gente que trabaja

con mucho esfuerzo y sin llevarse nada crudo que es lo que usted pretende hacer creer por encima de todas las cosas y queremos que los próximos gobiernos

de dedicar tiempo a su trabajo a sus despachos a su farmacia para dedicárselo a la ciudadanía y luego tiene que volver al lugar del que vino y ese modelo

no queremos unas instituciones a las que solamente puedan acceder funcionarios que no tienen qué perder o gente con recursos que solo tiene qué ganar creemos que debemos contar con más controles pero no queremos poner

le recordamos esto porque a usted parece que se le olvida muchas veces

a trabajar para que esta democracia imperfecta se pueda corregir pero sobre todo para que siga habiendo ciudadanos comprometidos y con propuestas para resolver los problemas

voy terminando presidenta por eso hemos presentado todas esas cuestiones que se engloban en nuestra enmienda de totalidad porque en realidad aunque usted pretendía ponerse estupendo se quedó muy corto y si ha leído la enmienda que creo que sí verá que

pero no se engañe todas esas medidas señor maneiro voy terminando presidenta

están muy bien y además van de suyo pero no son la varita mágica por la que pluf desaparece la corrupción

no eso tiene que ver mucho con la opacidad con la roña apreciación de lo que es

con las miserias humanas señorías y eso solamente se soluciona con transparencia con transparencia y con más transparencia y sobre todo con decencia con la colectiva y con la propia y le adelanto que el grupo socialista votará su enmienda gracias por su amabilidad

como para recibir regalos y hacerlos yo le recomendaría al señor maneiro que entre

las cosas que usted pida a quien se las pida al olentzero papa noel o a los reyes magos incluya un libro que hace años leí no para que lo tenga en

lo han leído porque la prudencia suele ser y la humildad suelen ser al menos dos de los requisitos importante también no solo en la vida sino específicamente en el ejercicio de la política

sobre todo porque usted tengo la sensación que tiene la piel

cuando se refiere a los demás y no se puede ser tan sensible cuando se reciben las críticas y tan contundente a veces

yo no sé qué insultos y descalificaciones dice usted que ha recibido en esta cámara o en otros sitios

pero es difícil que alguien pueda venir a lamentarse sobre insultos y descalificaciones recibidos cuando

o antes en ese mismo discurso nos acusa a los partidos políticos de fomentar la corrupción literalmente usted ha acusado a los partidos políticos

que de fomentar la corrupción eso es profundamente injusto y además y permítamelo políticamente mezquino también usted ha dicho que no vale las lágrimas de cocodrilo y no sé a qué se refiere

y ha dicho que hay que hacer de todo menos estar de brazos cruzados también upyd se caracteriza en demasiadas ocasiones por ese adanismo en virtud del cual

la política moderna se inventa con la llegada de ustedes al arco parlamentario o a la política nacional o a la política vasca esa soberbia

también menospreciando y también insultado y eso sí que es un insulto al resto de parlamentarios en esta cámara

no lo creo no creo que haya ningún político al menos en esta cámara

que esté encantado con que haya corrupción el problema es de aquellos que están encantados

para intentar obtener algún beneficio particular y partidista que son dos cosas completamente diferentes

en una en la que insta al congreso de los diputado y al gobierno de la nación a que impulse determinadas medidas contra la corrupción

de medidas para instar al gobierno vasco a que implemente determinadas medidas y políticas o reformas legales

la corrupción aquí en euskadi sería bueno señor maneiro también que usted que tiene además de buenos asesores se suele preparar los temas

que el gobierno de la nación y el congreso de los diputados tiene que legislar sobre determinadas materias que ya están en tramitación en el propio congreso de los diputados

ya se han aprobado en el congreso de los diputados pero le voy a enumerar para iluminarle algunas de las medidas que están en tramitación ya en el congreso de los diputados hay dos como son proyecto de ley orgánica de control de actividad económico financiera de los partidos políticos la ley

hay modificaciones del código penal y ahora se las voy a especificar señor maneiro

y modificaciones de la ley de enjuiciamiento criminal para agilizar los procesos de corrupción también en tramitación en el congreso de los diputados y me van a perdonar si les aburro pero creo que es importante también que

acusa a la política o a los partidos políticos de estar de brazos cruzados

fomentar la corrupción a los partidos políticos todos menos upyd

en relación con funcionamiento de los partidos políticos se está tramitando una modificación también

el órgano superior por ejemplo se renueve mínimo cada cuatro años para que el procedimiento se suspensión de militancia de aquellas personas

de sufragio pasivo para que estas cosas no estén al arbitrio de los partidos políticos y otras muchas más en cuanto a la financiación de los partidos políticos señor maneiro se va a prohibir las donaciones

se va a prohibir las condonaciones de deuda a los partidos políticos por entidades de crédito se va a prohibir la concesión o negociación de créditos en condiciones más ventajosas que las de los mercados

se va a imponer la reducción de cincuenta mil euros el límite de donaciones de personas físicas a partidos políticos se va

se va a imponer la publicación en la página web de los partidos políticos de todas las donaciones superiores

euros se obliga a las entidades de crédito de informar anualmente al tribunal de cuentas a las entidades de crédito informar anualmente al tribunal de cuentas sobre las donaciones ingresadas en las cuentas de los partidos se regula legalmente la obligatoriedad de un acuerdo del consejo de ministros para subvenciones a partidos políticos de más de doce millónes de euros

incluyendo el balance y cuenta de resultados créditos pendientes de amortización con especificación de la entidad concedente

y donaciones que ahora habrá que publicar se obliga al responsable de la gestión económica financiera de los partidos políticos

informe por parte del tribunal de cuentas se prohíbe expresamente que se reciban directa o indirectamente donaciones de organismos empresas o entidades

ahora estoy hablando de las fundaciones también de los partidos políticos se impone también la fiscalización del tribunal de cuentas de la actividad económico financiera de las fundaciones y entidades vinculadas en cuanto a fiscalización y sanción

como personas jurídicas se incorpora señor maneiro no ha dicho usted toda la verdad se tipifican con infracciones muy graves graves y leves

y plazos de prescripción de esta responsabilidad penal de los partidos políticos y ahora estoy hablando como entenderá de la modificación del código penal

por la agencia tributaria esto que vulgarmente dice que el que la hace la paga

en cuanto a la regulación al control de la retribución

se impone un mayor detalle a la publicación de la declaración de bienes e intereses de los altos cargos

limitación y control sobre los gastos de representación que hasta ahora no existía señor maneiro se prohíben las tarjetas de crédito a cargo de la administración para pago de gastos de representación

en cuanto a las medidas penales y procesales además de la tipificación expresa como delito de la financiación de los partidos políticos se amplía los plazos de prescripción de estos delitos en los supuestos más graves en los que se prevé que la inhabilitación

diez años se incrementa la duración de las penas de inhabilitación para los delitos más directamente vinculados con la corrupción

se fija un plazo máximo de instrucción de los procedimientos penales y aquí estoy hablando de la modificación de la ley de enjuiciamiento criminal hay una nueva regulación

para facilitar precisamente la recuperación de los activos mediante la introducción de presunciones y modificación de la carga de la prueba ahí es nada se crea la oficina de gestión y recuperación de activos derivados del delito

me voy a quedar sin tiempo para acompañar mi intervención de algo más

en las medidas contra la corrupción qué han hecho estos señores de upyd vamos a recuperar también

upyd votó en contra de la ley de transparencia upyd

upyd votó en contra de eliminar las indemnizaciones al cese de los cargos directivos del sistema financiero

upyd no votó a favor de la reforma del código penal en materia de transparencia y de lucha contra el fraude fiscal upyd pide un pacto de estado en esta materia pero se ha desmarcado prácticamente de todas y cada de las medidas

para atajar la corrupción y para avanzar en transparencia a no ser

no quiera un pacto de estado a no ser que upyd no quiera simplemente medidas contra la corrupción porque lo que quiere

que lo que viene a decir es que la corrupción está institucionalizada y eso es rotundamente falso hay casos de corrupción sangrantes

de esta cámara y de la presidenta los partidos políticos no hemos racionado siempre bien y a la altura de esos casos de corrupción asquerosos también es cierto nos hemos equivocado en el pasado sin duda nos hemos equivocado en la reacción ante determinados casos de corrupción cierto pero de ahí

ante la ciudadanía de que la corrupción es generalizada y está institucionalizada hay un abismo y ante todas las medidas que en el congreso de los diputados se han

en contra y para terminar señora presidenta hemos presentado una enmienda porque en euskadi nosotros creemos

manera de afrontar con serenidad con rigor y de una manera sensata y realmente eficaz este fenómeno es a golpe de moción

nosotros creemos que con seriedad con rigor y con determinación

una ponencia parlamentaria que analizara en plazo breve las medidas a implementar contra la corrupción también en euskadi con sus consiguientes reformas legales también en euskadi y eso sí que está en nuestra mano señor maneiro y en la suya

va a votar también en contra la mejor medida contra la corrupción señora presidenta y termino no son solo las reformas legales que también no son solo las reformas legales

si dejamos de actuar con responsabilidad a esa responsabilidad nosotros le llamamos también a usted señor maneiro muchas gracias eskerrik asko sémper jauna

representaban todos los intereses espurios de la representación pública

a las cuales les conceden obras multimillónarias y que estas devuelven sus favores con creces dándoles financiación para sus partidos les decía también que ustedes representan al sector financiero corrupto especulativo y salvaje

les achacaba también que ustedes en el fondo se protegen entre ustedes como están haciendo ahora y por el contrario a la policía para golpear a las personas que protestan contra las desigualdades y las corruptelas o directamente utilizan la policía para secuestrar a otra joven vasca entregándola al sistema carcelario torturador español es decir
utilizan los medios de la fuerza pública no para defender a la ciudadanía mesedez isiltasuna eta lópez de munain mesedez

utilizan los medios de la fuerza pública no para defender a la ciudadanía de aquellos que quieren robarles sus derechos sino que la utilizan para defender el carácter privado de la propiedad

a eso ustedes le llaman velar por la seguridad hori guztia esaten nizuen osoko bilkura hartan

herritarrok jada ez dugu sinesten partxeetan creemos que no es momento de hablar de leyes de transparencia ni de compromisos etéreos ni de hacer frases grandilocuentes

que sería positivo debatir sobre este punto de vista no sé si en una ponencia como pide el grupo popular u hoy en este debate

y sin razón aparente en este modelo de representación política

la corrupción es la consecuencia de un sistema corrupto que ha podrido todas las estructuras sobre las que se sustenta el poder democrático representativo también en euskal herria vivimos una época complicada en lo político en lo social y en lo económico la ciudadanía no solo tiene necesidades sino que las administraciones públicas han decidido no atenderlas

prioriza los intereses privados de una minoría por encima de los intereses públicos de laciudadanía así hemos visto ir desapareciendo el peso de lo público en la economía a través de las privatizaciones algunos lo llaman eficacia en la gestión mienten deberían llamarlo de lo público privatizaron para posteriormente vender a precio de saldo los sectores estratégicos más rentables aquellos que daban un servicio básico

pueden pagar ni tener acceso a él ejemplo la pobreza energética para euskal herria bildu los derechos no se privatizan más bien al contrario deberían ser recuperados

gestionando necesidades sociales es momento de poner todos los sectores estratégicos al servicio de la ciudadanía con esto posiblemente dejaríamos de ver

energéticas o de la construcción cobrando sueldos millónarios como decía

la teoría de la acumulación del capital hoy se completa con la acumulación del poder político con la acumulación del poder productivo mercantil de medios de comunicación financiero de la seguridad etcétera esta crisis está llevando a que el poder se concentre al igual que el capital en menos manos los medios de comunicación cada vez menos libres se concentran en una elite

y acumula el poder financiero y productivo esta teoría de acumulación se demuestra con datos perfectamente y es la base del problema de la corrupción política para que el poder actual de los sectores económico financieros pueda sentirse seguro en sus sillones

nunca habíamos sido menos libres como lo somos ahora pero seguramente el ser humano nunca se sintió tan libre

los que hacemos las leyes lo somos aquellos que hemos sido elegidos por la sociedad entonces cómo puede ser que la sociedad elija

pues no lo hace la sociedad enseñada engañada y desinformada bajo el yugo de que el hecho de votar significa directamente vivir en democracia elige

la mayoría de ellas continuistas y defensoras del régimen oligárquico del poder por ello cada vez que en el estado español se habla de posible cambio de políticos salta como un resorte la defensa de una gran coalición entre el partido popular y el partido socialista obrero español aquí algo semejante entre el partido nacionalista vasco y el partido socialista de euskadi para buscar una supuesta centralidad política frente a aquellos que conformamos la verdadera coalición de cambio

esta gran coalición y no la suya compite por recuperar el poder político para devolvérselo a aquellos que nunca debieron

kanpainen finantzazioarekin alderdien finantzazio irregularrekin la corrupción decía es la base de aquellos que defienden los intereses de los privilegiados

es el pago con las puertas giratorias con financiaciones de campañas con financiaciones irregulares de partidos es el pago a la servidumbre y a la sumisión no escapemos de estos debates de profundidad y nos vayamos a debates superficiales la corrupción

esta es la tesis que defendemos seguro que ustedes podrán citar casos de corrupción en otros modelos políticos y seguro que en algunos de los casos serán ciertos si bien

a cuestionar ya que en estas alternativas políticas está comprobado que es la clase trabajadora la que ha conseguido más avances en sus condiciones y derechos que las clases dominantes por ello el bien público predomina frente a lo privado eso debe mover a la política y nada más

muy preocupada por la corrupción política que existe tanto en euskadi como en españa este es un hecho que creo que no debería negar ningún representante de ningún partido político

el cuarenta por ciento de la ciudadanía cree que hay corrupción en el gobierno vasco el propio fiscal superior del país vasco hace algunos meses dijo que en euskadi

esto es así y a los hechos me remito la señora gallastegui y en general todos los portavoces pero quizás especialmente la señora gallastegui y el señor sémper se ponen

o todo lo que debía hacerse para enfrentar la corrupción política ya se está haciendo y se me dice que pretendo ser el látigo de todos y yo lo que he hecho ha sido describir los hechos que han acontecido en el conjunto del país en los últimos tiempos ustedes no se han enterado que hay corrupción política y en el conjunto de españa no se han enterado que se ha producido corrupción política como consecuencia de que sus partidos políticos principalmente no han movido un dedo para luchar contra ella y usted señora gallastegui ha hecho un alegato en favor de la actividad política

y de los ere de andalucía de todo esto es de lo que yo he hablado

política que han sido posibles como consecuencia de que los principales partidos políticos no han movido un dedo para acabar con esa lacra me decía el señor sémper qué es lo que ha hecho upyd en los últimos tiempos contra la corrupción política mira

que afectan también al partido nacionalista vasco y al partido socialista obrero español y al partido popular estos son sus hechos sus hechos son estos

lleva anunciando tres años no sus hechos son los casos de corrupción política y su voto contrario a todas las medidas planteadas por upyd para acabar con esa lacra evidentemente yo también hago un alegato en favor de la política y de la buena política y de la política decente

a la cosa pública pero es evidente que la corrupción política señor sémper a día de hoy en españa esta institucionalizada es un hecho

la corrupción es mezquino y me acusa de

lo único que he hecho ha sido describir los hechos ocurridos y esto debe ser soberbia y debe ser mezquino por qué ha habido tanta corrupción política en españa qué es

hombre evidentemente no ustedes la han fomentado claro que la han fomentado la han fomentado desde el momento en que ustedes han protegido a sus propios corruptos

desde el momento en que han votado en contra de todas las iniciativas planteadas por upyd para acabar con esa lacra desde el momento en que se niegan a sacar sus manos de la justicia estos son los hechos y esto demuestra que ustedes de esa forma lo que han hecho ha sido

ustedes de manera personal sino los propios partidos políticos que nos han gobernado durante estas décadas han permitido estos

upyd ha votado en contra de no sé qué medidas claro porque nos parecían claramente insuficientes como puede ser la ley de transparencia en contra de medidas que eran simples parches y porque eran insuficientes para acabar con esa lacra ya lo último que me faltaba por oír es que el partido popular

ese pacto de estado ya existe es el suyo el que tienen ustedes para que nada cambie y no se haga todo lo posible para luchar contra la corrupción política ese es el pacto que ha existido en españa durante los últimos años el pacto suyo firmado para protegerse ese es el pacto nosotros cómo vamos a firmar un pacto de estado

que no mueven un dedo para luchar contra esta lacra nosotros lo que proponemos son medidas y medidas porque esa es la forma de hacer política por eso he traído yo este debate

un hecho evidente que este problema hay que solucionarlo y que se soluciona con buena política yo no he venido aquí a acusar personalmente a nadie yo he descrito

y todas estas medidas no se han hecho porque ustedes no han querido y nosotros décimos que hay que hacerlas cuanto antes y podemos hablar de más transparencia y podemos hablar

de que ustedes saquen sus manos de la justicia para que sea realmente independiente no promesas que el señor rajoy lleva haciendo durante tres años sino hechos concretos porque

aprobada a día de hoy no está aprobada ninguna de esas medidas es más cuando propusimos algunas de esas medidas algunas pocas se nos insultó en el congreso de los diputados la corrupción no está unida al sistema capitalista señor lópez de munain sino a la forma en que los partidos políticos tradicionales han actuado y gobernado

allí y aquí en el conjunto del país hay corrupción política

se nos dice que en euskadi no hay corrupción solo imputan de vez en cuando a cargos

o a amigos del partido nacionalista vasco y luego está la corrupción soterrada en definitiva una medida en positivo

a nadie sino que es para defender medidas concretas que nosotros consideramos indispensables para acabar con esta lacra esto es lo que he hecho yo política

denunciar los hechos y proponer medidas de calado para acabar con la corrupción política en lugar de

gracias presidenta antes lo he dicho señor maneiro que pensaba que había leído usted nuestra enmienda pero veo que no

veo que no la ha leído en absoluto porque el tercer punto que era el que se refería sobre todo

que hubo en el congreso de los diputados en el que se superaron con mucho todas esas iniciativas que usted plantea y que además copia igual que estos señores de aquí entonces

por lo menos léaselo y verá que entonces no tiene usted nada que decir respeto a que no tenemos nada que decir

también le decía otra cosa le decía que se había quedado usted corto y efectivamente se ha quedado usted muy corto porque siempre va a haber un señor lópez de munain que le vaya a superar a usted por la mano

por la mano pero que además se aprovecha exactamente igual usted que el aforamiento porque todo lo que dicen es acusar de delitos a los demás y que además que tampoco sepamos siguen sin renunciar a los mismos privilegios que dicen que tenemos los demás

vamos por ahí no pensaba yo entrar al trapo de esto pero el señor munain ha hecho referencia a ese debate que tuvimos en comisión

y yo le dije que me daría vergüenza llegar a cualquier acuerdo en este asunto con usted

y le voy a decir por qué porque usted habla de corrupción política y habla de corrupción política como si eso fuera lo que hacen solamente los demás a usted le parece que

político es corrupción política a usted la parece que una extorsión política es

a usted le parece que producir lesiones por motivos políticos es corrupción política a usted le parece que producir daños

por motivos políticos es corrupción política a usted le parece que

de la ciudadanía por motivos políticos es corrupción política a mí me parece que sí y esa es la peor de las corrupciones existentes usted podrá decir lo que quiera pero usted y otros como usted

subasteros de la corrupción y traficantes de la corrupción ustedes viven de la corrupción que dicen tener los demás y no se dan cuenta que el veneno lo tienen ustedes dentro por eso le vuelvo a decir para ser lo mismo e igual de clara que lo fui entonces que ustedes

de ustedes espero que no todos pero muchos sí están condenados que por cierto usted pide que los condenados por corrupción política no puedan estar en los parlamentos

que los condenados por corrupción política no puedan trabajar en la administración todos esos condenados están aquí

sus obligaciones con la justicia y con la sociedad sí pero condenados y usted está pretendiendo lo mismo

y es que el gobierno se personará

los gastos y todo el daño que se hizo estoy de acuerdo con usted

pueden ustedes aquellos condenados a pagar todo el daño que hicieron a las personas a las que mataron y a las que dejaron aquí

todo el daño que hicieron a los negocios que destrozaron todo el daño que hicieron con las lesiones que causaron a gente que pasaban por allí porque tuvo la mala suerte

a dar clases de democracia a nadie absolutamente a nadie porque ustedes no están legitimados para eso y si no les gusta

no sé qué hacen ustedes aquí porque esto

intentar hacer creer que ustedes son la madre del cordero me refiero a lo puro

y eso no se lo cree ni dios es decir ni dios ni la madre de dios que también es la madre del cordero así que por favor

un poquito de por favor porque si no vamos a estar aquí usted y yo

pero cuando venga el juicio final es posible que se vaya usted a los infiernos y no tenga

cuando hay que reconocerlas señor lehendakari que antes

porque viene aquí a reclamar cosas insisto que ya están tramitando en el congreso de los diputados y le he hablado de la reforma

le he hablado de la reforma del código penal le he hablado de la reforma de la ley orgánica que afecta al funcionamiento de los partidos políticos le hemos hablado de la ley de financiación de los partidos políticos pero le da igual usted impasible el ademán

no es cierto sabe usted que

consejo de ministros de esta legislatura se aprobó la ley de financiación de partidos políticos sabe usted

cruzado de brazos no es cierto eso es radicalmente falso pero cuando uno

para tener la legitimidad a la hora de dar lecciones a los demás y usted pertenece a un partido político queefectivamente es relativamente nuevo y efectivamente no ha tenido cuotas de responsabilidad política

es verdad de gestión de poder es cierto pero su presidente creo que es presidenta o secretario general o como le llamen ustedes

sabe usted ha pertenecido a un partido político que como los demás le han afectado cosas y le han afectado casos de corrupción

ante casos de corrupción flagrantes que le afectaron yo no conozco ni una sola intervención ni una señor maneiro

cuando uno viene a esta tribuna o a cualquier lugar a intentar dar lecciones a los demás por lo menos tener cierta legitimidad

y el señor lópez de munain que de verdad

y tan viejo es que nos viene aquí a hablar prácticamente de las bondades del comunismo y de las democracias asamblearias alguien tan joven

y el señor matute y le han dado algunas indicaciones luego espero que sea capaz de reproducirlas bien pero claro

que cuando se introduce en un grupo que no le corresponde tiene que demostrar más radicalidad que los autóctonos

y claro usted y algunos otros de este grupo no son pura sangre para determinados

semejantes barbaridades porque claro venir a decir aquí que la corrupción está asociada al sistema capitalista a las democracias liberales de occidente y quedarse tan ancho

que defiende venezuela cuba china irán donde todo vamos es conocidísimo que no existe corrupción

del mundo institucionalizada la corrupción por una élite eso sí todos con camisas rojas que es eso lo que les identifica una élite absolutamente corrupta y corrompida usted viene a decirnos aquí que el sistema en el que vivimos es el más corrupto

el sistema en el que hacemos política que nos permite venir aquí a gente que pensamos de una manera diferente

que afectan a la vida de los ciudadanos es el mejor sistema conocido en la historia de la humanidad porque todos los demás sistemas han fracasado y es inaceptable

porque defienden sistemas que han fracasado allí donde se han implementado todo lo que no es democracia representativa

garantizan que los ciudadanos tengan libertad derechos con las imperfecciones que tiene el sistema por supuesto y que hay que ir mejorando y puliendo

o es que nos quiere decir que los populismos latinoamericanos son mejores que el sistema en el que vivimos eso es lo que nos quiere decir o nos quiere decir que el sistema post comunista chino es mejor y garantiza más libertades que el sistema en el que vivimos o que ese capitalismo de estado extravagante ruso por ejemplo tiene más libertades que el sistema en el que vivimos o que el sistema por ejemplo

tiene más libertades que el sistema en el que vivimos nosotros aquí cuál

cuál es su modelo cuál es menos corrupto per se por naturaleza cuál garantiza más libertades al ciudadano que este sistema en el que vivimos cuál

díganos cuál es su modelo esa supuesta arcadia feliz que se convierte en tortura

allí donde simplemente y ahí donde triunfa esa es la realidad y este sistema necesita de ser modernizado y mejorado

precisamente se dotan de legitimidad cuando progresan cuando evolucionan cuando se adaptan a los tiempos porque son

y para evolucionar ningún otro sistema en el mundo ha demostrado tener la capacidad de evolución que tiene este sistema porque este país no era igual que hace treinta años y sus instituciones y nuestras leyes no son las mismas porque han sido capaces de evolucionar y hoy estamos en un momento necesitamos de una nueva evolución de un nuevo salto no de una ruptura no de una marcha atrás

y somos los demás y por eso apelábamos nosotros a su responsabilidad

es que una ponencia en la que podamos sentarnos reflexionar compartir desde la sensatez y desde la seriedad desde el rigor político qué medidas podríamos implementar en euskadi qué reformas podríamos hacer en euskadi para intentar evitar esos resquicios a la corrupción que como no estamos tocados por ninguna varita mágica no estamos exentos

yo estoy absolutamente convencido que en esta cámara hay una mayoría de parlamentario una inmensa mayoría de grupos parlamentarios que afrontarían ese debate en esa ponencia

necesario y exigible con esa seriedad y con esas ganas de que nuestro sistema siga evolucionando siga modernizándose y siga dotándose de las herramientas necesarias no solo de prevención sino también de reacción contundentes por eso les vuelvo a pedir una vez más aunque sepa que es predicar

que apoyen la enmienda del partido popular constituyamos una ponencia en esta cámara implementemos o intentemos ponérselo cada vez más difícil a los corruptos a la

que en este caso no soy yo lo que sí es una suerte tener tres minutos más

de aquello que se me ha dicho que es con los que ha contado el señor sémper en toda su intervención ponía usted

de ejemplo que el estado español o si el estado español y la democracia española o el sistema democrático español es uno

podría ser yo le digo sufrimos al estado español y ayer mismo

apareció un artículo en prensa en el que se decía que el estado español estaba entre los últimos en libertades

es de los pocos junto con azerbaiyán y otros grandes países

que no dejan a las autoridades internacionales hacer una revisión de cuáles son

sus datos a la hora de hablar de libertad y ahí se hace una revisión tanto de los juicios periódicos abiertos cierros de periódicos

eso el estado español nunca lo ha permitido hacer nunca eso es la democracia

no se preocupe si quiere ya le paso el artículo

sobre el discurso o sobre mi persona que se ha podido hacer hoy por parte de algunos portavoces lo que se quería plantear eran varios puntos que nos parecían importantes uno

de lo público por parte de las instituciones ahí no podemos estar de acuerdo con el señor maneiro ya que lo que pretende es la despolitización total de la administración pública

aumentar el control que debe existir sobre las instituciones por parte de los partidos políticos que

representamos de una manera en este caso la representativa a la ciudadanía existen multitud de otras maneras para representar a la ciudadanía

con la democracia representativa tan compatible como lo son otros modelos representativos otro de los puntos que queríamos traer hoy era el de abrir los espacios de participación a la ciudadanía es decir todo aquello que se la ha robado todos los derechos y todos los espacios que han sido

gracias a todos ustedes a la hora de acceder al dinero público recuperarlo para la ciudadanía ustedes han vendido la administración pública todos ustedes la han vendido la han subastado y la han regalado

todos ellos son los que se han visto beneficiados del mayor

del mayor expolio cometido que es el de las privatizaciones de lo público

la necesidad de sacar de los órganos de decisión pública los intereses de los lobbies económico financieros y se vuelve a ver

ustedes responden a una y responden fortaleciendo o intentando hacer fortalecer de esta manera el propio sistema no cuestionando el modelo

la ideología se la dejaron apartada hace treinta años y ahora mismo ya representan directamente aquello que es el partido sin ideología que se mueve en un espacio

el liberalismo y la democracia cristiana pero es que ustedes no encuentran su espacio porque de izquierda no les queda absolutamente nada y esa pérdida de ideología esa pérdida de ideología es lo que les hace ir dando tumbos y aceptar uno el sistema y aceptar que sea la propia ciudadanía la que se vea empobrecida

había recogido bien las palabras de mis compañeros de bancada pues así también funcionamos en euskal herria bildu y esa es la diferencia podemos ser si lo quieren llamar así voceros de la ciudadanía incluso voceros de grupo lo que no somos es voceros

ni de bancos ni de empresas ni de aquellos que pretenden empobreciendo a la ciudadanía todos ustedes sí lo son y esa es la gran diferencia entre euskal herria bildu y el resto de ustedes y a eso me refería cuando existe

que sí que es alternativa mientras que ninguno de ustedes podrán serlo ya que no se cuestionan ni mucho menos el modelo se hablaba también que desde el estado español se estaba haciendo una tramitación de no sé cuántas leyes claro el problema es que lo que se dice es cuántos años se lleva para tramitar esas leyes

a hacer y no hacer absolutamente nada porque no le interesa porque todos los casos o la mayoría casi el ochenta por ciento de los casos que van saliendo pertenecen

interna es intrínseca a su partido por una razón defienden los intereses de aquellos que están ocupando los espacios de decisión pública defienden los intereses de esa minoría privilegiada también se nos decía

con euskal herria bildu debido digamos a cuál es su suelo ético dónde ponen ustedes su suelo ético

su suelo ético lo ponemos a dos metros bajo tierra y lleno de cal ese es su suelo ético y esa es la ética que ustedes representan y para terminar decir que cuando nos comparamos permanentemente

directamente con los perdedores directamente españa no es algo con lo que podamos compararnos o no debiéramos compararnos

que en el estado español no es ponernos medallas todo lo contrario aceptar eso es directamente decir que en todos

en los que vamos a tratar la corrupción se va a tratar de la misma manera que no es otra que la de esconderla y ya siento yo no haber sido o no ser de la altura

o alguien de los que manda por lo menos podría ser alguien de confebask o directamente

no ha sido una comparación de quién tiene más no sino que hay un interés político por parte de los partidos constitucionalistas

en todas las declaraciones que nos hanacompañado durante el verano de ligar la corrupción también y buscar un sujeto en euskadi porque claro lo demás no sale la ecuación entonces hace falta también un sujeto afectado por la corrupción

le resuelve una parte del problema porque dice todos son corruptos también el pnv porque a la izquierda abertzale de tanto buscar y buscar y buscar y rebuscar

después de treinta y tantos años en corresponsabilidades institucionales

no encontrar y buscar y rebuscar y rebuscar y no encontrar y sabéis lo que os ha pasado

se ha pasado la legislatura y se os ha olvidado gobernar donde estabais gobernando

porque seguís buscando los de la ap uno que venimos de gipuzkoa

que hay dos túneles en este momento cerrados

en este momento se está procediendo a hacer catas en los túneles

se corresponde con la factura cuatro años y pico después haciendo catas en los túneles

ese es el estilo esa es la construcción nacional el gure bidea euskal bidea